tampoco es mi intención en este turno pero sí la de exhibir cuando menos el texto de la ponencia para la paz y la convivencia en el parlamento vasco suscribo desde el primer punto

el diagnóstico que usted hace o bien no lo tiene

contrastado con el texto o algunas de sus aseveraciones creo que pueden evidentemente encajar o rozar con la literalidad

no voy a dedicar mis cinco minutos a leer pero la propuesta de principios y compromisos

se constituya o no nuevamente la ponencia también eh bildu ha manifestado sus distancias o su posicionamiento vamos a decir crítico

de este texto tiene problemas eh bildu por que sería muy esclarecedor por lo tanto ocasión vamos a tener

con qué pronunciamiento bien sea básico ético o los específicos o la garantía de no repetición compromisos específicos compromisos democráticos tiene problemas eh bildu esperaremos a sus aportaciones en el debate

que si se quiere la disolución de eta hay que prepararla primero verificar la autenticidad de su decisión alguien lo tendrá que hacer ustedes dicen no se tienen que disolver y las fuerzas policiales se encargan de eso

si la voluntad es inequívoca la de la disolución existirá un protocolo para que eso suceda por lo tanto ahí hay una primera responsabilidad

que debe ejercitar debe ejercer esa es su responsabilidad y decía que junto a esa decisión habrá que incorporar otras que están incluidas como trabajos a desarrollar también por esta ponencia pero

que argumenta la proposición no de ley que usted trae a esta cámara efectivamente busca más el posicionamiento o reposicionamiento

por lo tanto la condena y la disolución y usted sabe

en esta cámara se puede hablar de la condena de la historia criminal de la manera que usted quiera usted puede presentar una y mil veces la misma propuesta no van a votar ninguna de las veces la condena han rechazado como bien conoce la violencia además específicamente la de eta incluso se ha incorporado a estatutos de sortu por lo tanto

en el pasado no sé en qué trinchera y a futuro evidentemente sin olvidar lo que ha sucedido

y nosotros por eso en nuestra enmienda hablábamos

en primer lugar el reconocimiento del daño causado y por supuesto de la responsabilidad que es intransferible de todas

que hay que identificar esa responsabilidad que no

tampoco impunidad pero también hay que establecer un proceso un procedimiento un protocolo

esa es la petición que hacemos nosotros si sale adelante bien y si no pues nos encontraremos no sé si es una ponencia o nuevamente en un debate similar o de unas condiciones muy parecidas

esta mañana con este tema por lo tanto nosotros seguiremos manteniendo nuestra enmienda de totalidad y evidentemente votaremos en contra de las demás
espero que esto no nos abra un proceso de ilegalización eskerrik asko egibar jauna

nos temíamos que el planteamiento que hoy se traía por parte del partido popular era el de utilizar esta

lo hemos podido comprobar se nos habla de déficit de legitimidad no sabiendo

ni siquiera les ponemos a ustedes en ese brete hablan ustedes de futuro pero parecen estar anclados en el pasado un pasado que todos estamos haciendo y desde luego esa bancada de la izquierda está haciendo unos esfuerzos ingentes

nos interesan los hechos nos interesa mucho lo que ha sucedido

sin memoria sin embargo no nos interesa tanto las valoraciones que cada cual pueda hacer de ese pasado por supuesto que es interesante saber cuál es el posicionamiento de cada uno cada uno tendrá su relato cada uno tendrá la valoración a hacer a ese pasado del que hoy en día nos urge salir avanzar hacía el presente y hacia el futuro eh bilduk aitortzen du inolako salbuespenik gabe urteetan gure herriak

a ver volvemos a empezar

resultado de la votación setenta y cinco votos emitidos veintisiete votos a favor veintisiete votos en contra veintiuno abstenciones ondorioz hurrengo plenoan bozkatuko da ere

presidenta la llamada lth establece las relaciones y el reparto competencial entre las diputaciones y el gobierno vasco en virtud de esta ley del resto de la legalidad vigente cada territorio no solo tiene su propio parlamento y gobierno y su propia hacienda sino que además recauda sus propios impuestos y regula su política fiscal siendo esta la realidad de los hechos en nuestra opinión en opinión de upyd no se entiende no es razonable que una comunidad autónoma

tenga nada más y nada menos que cuatro parlamentos y cuatro gobiernos tres políticas fiscales o tres haciendas máxima en un tiempo de crisis económica

una sola política fiscal en el conjunto de la unión europea como medio para salir mejor y de manera más justa de la crisis

y vista la experiencia acumulada de estos treinta años la llamada ley de territorios históricos facilita sin ningún tipo de dudas que se produzcan múltiples y graves

sobredimensionamiento de estructuras y conflictos interinstitucionales

por lo que proponemos con esta iniciativa su profunda reforma

anclada en la historia pasada no pueden existir leyes sagradas no hay leyes sagradas ni la constitución española

pero tampoco la ley de territorios históricos son leyes que son perfectamente cambiables

que dé pasos en esa dirección y nosotros como ya lo hicimos en la pasada legislatura volvemos a poner encima de la mesa la necesidad de reformar la ley

son favorables a la modificación de la ley de territorios históricos o si prefieren dar otra vez un paso hacia atrás para constituir una ponencia que alargue

este debate que nosotros pensamos que es absolutamente urgente la reforma de la lth desde luego no es la panacea

pero sí creemos que es absolutamente indispensable para modernizarnos internamente y mejorar el bienestar de los ciudadanos a esta reforma deberían unirse otras medidas como la aprobación y puesta en marcha de una ley municipal o la reducción drástica del entramado de empresas públicas entes y fundaciones dependientes no solo del gobierno vasco sino también

o de los diferentes ayuntamientos y desde luego debe fructificar y fortalecer una nueva cultura política que se caracterice por el uso razonable y sensato de los dineros públicos frente a qué hay de lo mío o

yo creo que sería interesante que la situación de crisis económica nos abriera los ojos de una vez

nos impulse a impulsar las medidas cambios legales que sean necesarios para al final vivir mejor

del año dos mil once este informe decía que el complejo entramado institucional vasco genera incomodidades burocráticas y desigualdad entre los ciudadanos

de numerosas políticas públicas según ese estudio que presentó hace dos años hace año y medio el gobierno vasco esas ineficiencias

al menos cuatrocientos millónes de euros anuales además como digo de desigualdad entre los diferentes ciudadanos vascos este informe que fue analizado y debatido durante la pasada legislatura así como los trabajos de la comisión de estudios sobre duplicidades e ineficiencias y sobre todo la experiencia acumulada de todos estos años han venido a confirmar nuestra opinión sin ningún tipo de dudas que este entramada en un disparate

no solo para reducir los inmensos gastos administrativos que produce sino también y sobre todo para modificar y clarificar el reparto competencial y proceder a eliminar o redimensionar las instituciones que se demuestren innecesarias los ciudadanos

institucional que padecemos los ciudadanos vascos en la actualidad como si fuera algo venido del cielo que no pudiera cambiarse yo creo que este parlamento tiene la suficiente autoridad como para poder decir al gobierno que traiga esta entre todos modificar la ley de territorios históricos y hacerla más viable y poder tener el mejor entramado institucional posible en fin esta es nuestra iniciativa ya digo instar al gobierno vasco a incluir en su calendario legislativo y presentar en la cámara en el plazo de seis meses el proyecto de ley de reforma de la lth nosotros lo que hacemos en esa iniciativa es señalarle al gobierno vasco una serie de objetivos que debería cumplir esta reforma hablamos de eliminar las duplicidades

las ineficiencias y las distorsiones que se producen en el ejercicio de la actividad político administrativa

por el sobredimensionamiento injustificado de las administraciones optimizar el gasto y la distribución equitativa de los recursos públicos racionalizar modificar y clarificar

entre las diputaciones y el gobierno vasco y en definitiva prestar un mejor servicio un servicio más eficiente al conjunto de la ciudadanía

en este asunto nosotros trajimos esta

hace dos años a este parlamento y nos quedamos solos a pesar de que ya en esa época el partido socialista planteaba en su propio programa político la reforma de la ley de territorios históricos y en lugar de ello

durante estos meses pasados y por cierto por ahí han pasado

que han podido dar su opinión sobre el entramado institucional vasco

ha servido para mucho creo que esa ponencia ya dio todo lo que dio de sí creo que no hay mucho margen para escuchar cosas distintas

sabe qué modelo institucional quiere y por lo tanto se trata de que eso que se dice en determinados medios se aplique yo hace escasos días leía en un medio de comunicación que el partido socialista

durante el pleno de hoy en concreto durante el debate de esta iniciativa qué grado de compromiso tenía el partido nacionalista vasco con la reforma

para reformar la ley de territorios históricos el mismo que el suyo porque han firmado una enmienda transaccional para volver a poner en marcha una ponencia que ya funcionó la legislatura anterior obviamente si se constituye esa ponencia nosotros estaremos

y trataremos de poner sobre la mesa no solamente la reforma de la ley de territorios históricos sino otra serie de cuestiones que en nuestra opinión son absolutamente urgentes esta es la iniciativa efectivamente es clara es directa se trata de pedir al gobierno que presente la reforma de la ley de territorios históricos con esa serie

que compartiese la necesidad de reformar la ley de territorios históricos y que compartiese esos mismos objetivos al parecer no la hay pero en todo caso nosotros en el futuro seguiremos insistiendo porque pensamos

y en definitiva modernizarnos porque ya va siendo hora gracias

gracias presidenta compartimos muchos de los argumentos recogidos en la parte

en la base de la proposición no de ley presentada por el grupo socialista

las mismas fechas compartimos sobre todo la necesidad de que más allá de cuestiones históricas o competenciales las instituciones

ni agujeros negros de ineficiencia los socialistas sin embargo no creemos que el objetivo sea cambiar la lth sin más

para conseguir otros objetivos lo que tenemos que hacer es terminar de revisar cómo funcionamos

y cómo podríamos funcionar mejor desde cada ámbito institucional por ello el compromiso de trabajo

del entramado institucional no puede ser cambiar una dos o cinco leyes el objetivo es ser más eficaces y eficientes

a la ciudadanía planteamos que esta cuestión se debata en un foro específico en una ponencia en este parlamento

el cuándo que sea ya al principio de esta legislatura y sin citas electorales a corto plazo que condicionen las posturas de unos o de otros y es verdad que no partimos de cero hay un importante trabajo ya realizado porque en la pasada legislatura

sobre política general se aprobó crear una comisión especial que analizara las duplicidades

esta comisión especial hizo un buen trabajo y en base a él contamos ya con la cualificada opinión de los máximos representantes de las diputaciones de los alcaldes de las capitales de alcaldes y concejales

y de personalidades que estuvieron en la construcción del modelo institucional de euskadi además de expertos en gestión pública administración

sindicatos etcétera opiniones cualificadas de las más diversas procedencias ideológicas

desde la diferencia en unos puntos en común hay carencias y duplicidades en la prestación de los servicios hay que adaptar

y hay que hacer las modificaciones legales que permitan resolver estos problemas aunque la comisión de trabajo

el importante nivel de intervenciones dilató la conclusión de las tareas y el adelanto de las elecciones impidió finalmente elaborar

que nos indicara las medidas concretas a llevar a cabo pues bien pensamos que la ponencia que proponemos es un foro apropiado

y añadir en su caso alguno más aunque los representantes forales y municipales

fijemos en esta ponencia un plan de trabajo establezcamos los plazos en los que queremos hacer las cosas

determinemos lo que vamos a hacer de cara al futuro y si lo que hay que hacer entre otras cosas es reformar leyes pues hagámoslo reformemos las leyes que haga falta

es una ley que nosotros entendemos que no es que sea conflictiva gustará o no pero como todo depende de cómo se aplique

a lo largo de tres décadas en aplicarla como si fuera una ley constitucional inamovible irreformable

y no es así es una ley ordinaria y por tanto modificable con las mayorías habituales en esta cámara de hecho

reiteradas veces la lth hace una atribución competencial alegando derechos históricos pero desde el respeto a la previsión constitucional que ampara los derechos de los territorios históricos no podemos refugiarnos en herencias del siglo diecinueve para no prestar servicios propios del siglo veintiuno

pongamos en marcha esta ponencia empecemos también a tramitar la ley municipal que los socialistas hemos traído a esta cámara

remita al gobierno en su caso su plan de reorganización de la administración pública vasca porque las ideas los debates y las propuestas confluyendo pero pongámonos sobre todo como reto

de los servicios a los ciudadanos con la mayor eficiencia este es el reto que nos tenemos que plantear sin prejuicios

y sin tampoco apriorismos con el único límite democrático

a las mayorías y los procedimientos concretemos en esta ponencia las tareas necesarias para conseguir los objetivos resolvamos

definamos también los mejores sistemas de coordinación interinstitucional y realicemos los cambios legislativos que sean necesarios para conseguir los objetivos de eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos estamos comenzando la legislatura

y si tenemos voluntad política y empezamos ya esta legislatura podrá ser una legislatura que dé

y resolver muchas cuestiones que están pendientes desde hace demasiados años en euskadi muchas gracias eskerrik asko arriola jauna

zuk galdetu zenion si se trataba si existía la conveniencia o no

de la lth o si era necesario un cambio normativo y él le respondió literalmente que no que no hacía referencia a la reforma de la lth

y algunas de ellas tenían causas normativas y que había que analizar pero que no pretendía

como todos sabemos por anticipo de las elecciones no adoptó ninguna conclusión entonces

actualización o reforma del sistema institucional vasco y creemos además que hay que hacerlo permanentemente porque toda estructura pública debe estar al servicio de la sociedad las instituciones vascas están viendo un escenario de caída fiscales

pero no nos podemos limitar a la tesis de que hay que reformar o ajustar porque estamos en una situación económica en la que han disminuido la recaudación y los recursos disponibles tal y como se ha planteado por algún grupo queremos ir más allá y poder reflexionar entre todos sobre el modelo de país el modelo institucional o la administración que queremos tener tenemos que reflexionar con criterio

es verdad pero teniendo en cuenta también a la administración central del estado

por lo tanto puede que sea necesario llevar a cabo algunas mejoras o modificaciones no nos negamos a ello nosotros

muchas gracias señora presidenta este es un debate ya un tanto viejo en este parlamento
digamos que de novedad tiene poco pero yo sí quería

en el propio debate dejar claras dos cosas sobre todo para que no nos equivoquemos es decir la lth no crea ningún entramado institucional vasco porque no es así y la mala gestión no se corrige modificando leyes

pero si el que gestiona gestiona mal evidentemente las leyes seguirán diciendo lo que dicen pero la gestión

y otra cosa es el discurso que el señor maneiro nos hace es decir cuando el señor maneiro lo que está planteando es que no le gusta que haya parlamentos forales no le gusta que haya impuestos distintos en los territorios todo eso no viene en la lth que es el debate que usted nos ha traído hoy aquí

por cierto sorprendentemente bildu ha salido

de los derechos históricos primera novedad en esta legislatura que esperemos

eso viene donde viene y no viene en la lth por lo tanto si el señor maneiro lo que estaba pretendiendo

de hecho lo que usted nos pedía era que se le insta al gobierno vasco a incluir en el calendario legislativo

con objetivos de eliminar duplicidades o solapamientos ineficiencias distorsiones sobrecostes que podemos estar todos de acuerdo

estábamos de acuerdo para nada en absoluto con toda su argumentación que poco o nada tenía que ver con esto de lo que estamos hablando

que lo hicieron unos profesores de la upv en el que lo que se decía era que es que el gobierno vasco estaba invadiendo competencias de las diputaciones y se producían duplicidades

que probablemente es la ley en este parlamento que más veces se ha modificado

directa o indirectamente desde luego en la última etapa del lehendakari ibarretxe siempre para quitar competencias a las diputaciones

para lo mismo y además para quitárselas a los ayuntamientos pero luego también hay un discurso cuando menos contradictorio por parte de bildu que le parece muy mal que haya impuestos distintos

porque si aplicamos su criterio coincide usted con el señor de upyd en que todo tiene que ser uniforme y todo tiene que ser igual

a lo mejor lo primero que hay que hacer es como más de una vez nos han planteado que lo primero que hay que suprimir son los estatutos de autonomía que crean duplicidades porque claro si todo el mundo tiene que ser exactamente igual en todas partes y luego usted se lía

y lo más cerca está muy bien para gestionar pero depende qué es para usted lo más cerca porque lo más cerca según su discurso ya no eran los ayuntamientos

lo más cerca para usted qué es dentro de lo que usted nos ha planteado como decía estábamos a favor de la propuesta

estábamos a favor también nos parecía bien la propuesta que hacía en partido nacionalista vasco de instar al gobierno una propuesta a esta cámara nos parecía bien

lo que proponían el psoe y bildu de crear otra ponencia otra comisión

cuando en realidad todo ese trabajo ya está hecho y a estas alturas

pues que la gente plantee las cosas de verdad y las que se planteen en serio y las discutimos en serio pero sobre un texto

del partido nacionalista vasco desde luego la peor de todas que os parece es la transacción a la que se ha llegado

la transacción a la que se ha llegado

la transacción a la que se ha llegado evidentemente nosotros no la vamos a votar a favor y nos vamos a abstener porque porque además de crear una ponencia

en qué no sé si ustedes van a retirar el proyecto de ley municipal que teóricamente va al pleno siguiente porque si van a crear una ponencia para estudiar la modificación de la ley de territorios históricos y la ley municipal

han presentado para que lo debatamos todos en esta ponencia estudiará todo ese entramado institucional y si no me quiere usted explicar para qué creamos una ponencia literalmente

si usted nos plantea que aprobemos la suya para qué quiere una ponencia

porque nos están pidiendo aquí una ponencia entonces aquí hay cuando menos

socialista nosotros como les hemos dicho estamos a favor de modificar la lth se ha modificado muchas veces quizás la que más

si es para mejorar bien si alguno está buscando otra cosa modificando la lth no se consigue modificando la lth no desaparecen las diputaciones no desaparecen las competencias

la ley del concierto si alguien está planteando modificar la constitución española pues ya sabe a donde tiene que ir a hacerlo y plantearlo

nosotros de los argumentos que hemos oído de los dos grupos que lo estaban planteando no estamos de acuerdo en ninguno de los dos casos y por lo tanto votaremos en contra de eso aquí con ponencia sin ponencia y en madrid con ponencia y sin ponencia y a partir de aquí

tendremos una nueva ponencia creo que era napoleón cuando queramos que algo dure mucho tiempo creemos una comisión creemos una ponencia discutamos mucho todo para que luego no se haga nada si es la conclusión de este primer debate sobre este tema en este parlamento pues que sea así ya que lo quiere la mayoría

ciertas sorpresas durante el debate de esta iniciativa porque cuando presentamos esta iniciativa en el registro

básicamente como seguro el voto en contra del grupo popular y resulta que ha sido al grupo que más le ha gustado nuestra iniciativa por lo que he escuchado parece ser que el señor damborenea estaba de acuerdo oh sorpresa con modificar la sacrosanta ley de territorios históricos para alcanzar todos estos objetivos que nosotros apuntamos ahí

que con la modificación de la ley de territorios históricos no se conseguían esos objetivos si no que había que hacer otras cosas como mejorar la coordinación

que efectivamente se puede reformar la ley de territorios históricos y que se pueden alcanzar esos objetivos nosotros efectivamente no hemos propuesto aquí la supresión de las diputaciones forales o la supresión del concierto económico

tanto la supresión de las diputaciones forales como la supresión del concierto económico porque defendemos por encima de todo la igualdad entre todos los ciudadanos pero no lo hemos propuesto hemos propuesto únicamente la modificación de la ley de territorios históricos que era

durante la ponencia de la legislatura anterior sino habríamos instado a modificar la constitución española y las disposiciones que fueran necesarias o el estatuto de gernika no lo hemos hecho podremos hacerlo quizás lo hagamos más adelante

la modificación de la ley de territorios históricos yo creo que en los últimos tiempos yo creo que prácticamente todos los grupos han asumido de una forma o de otra

es claramente mejorable incluso el grupo nacionalistas vascos en los últimos tiempos ha venido a decirlo parece ser que en lugar de proponer y llevar a cabo cuanto antes esta reforma lo que se hace nuevamente es crear una ponencia

ya existió durante la legislatura anterior ya comparecieron ahí distintas personas personalidades autoridades representantes públicos y ya pudimos escuchar la opinión de todos ellos de hecho tampoco vamos a engañarnos yo creo que las posiciones de los partidos políticos están ya marcadas se pongan en marcha

eh bildu pasa ahora a defender los derechos históricos

yo le recuerdo al señor maeztu que hace aproximadamente

el grupo aralar y upyd firmamos esta enmienda transaccional y nos quedamos solos por cierto en la votación el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que remita a la cámara el proyecto de ley de reforma de la lth con el objeto de adaptarse a las necesidades de la sociedad actual y prestar un mejor e igualitario servicio a los ciudadanos vascos eso

estaba de acuerdo en que había que modificar la lth para conseguir unos objetivos y firmamos esa enmienda transaccional también parece que en esto ha empeorado aralar defendía la reforma de la lth y ahora prefiere impulsar una ponencia

posponer el debate yo creo que estamos todos básicamente de acuerdo y ustedes los saben perfectamente bien

alargar el debate y lo que es peor posponer las soluciones esta ponencia para cuando se ponga en marcha será después del verano

de que cuando no se quiera hacer algo se cree una comisión y por otro lado el partido socialista ya digo que decía días atrás

que la suya otra vez crear una ponencia en la que no sé si también se hablará de la ley municipal no sé si ustedes van a retirar el proyecto de ley municipal que han presentado porque primero hay que analizar entre todos qué tipo de arquitectura institucional queremos en todo caso yo creo que son claras incoherencias nosotros nos mantenemos en nuestra coherencia

euskadi en el primer punto del debate de hoy

y en este caso estamos otra vez en lo mismo tratar de modificar esas leyes que producen en este caso solapamientos duplicidades gasto superfluo y desigualdad y esa es nuestra pretensión y seguiremos insistiendo en este pleno y en la ponencia si es que finalmente se

se refleja otra vez la realidad de los hechos de setenta y cinco parlamentarios hay un parlamentario que quiere modificar cuanto antes la ley de territorios históricos y el resto de partidos políticos independientemente de lo que digan sus propios programas

oportunidad perdida creo que llevamos años en este asunto creo que ustedes partidos de derechas y partidos de izquierdas en este asunto en concreto son todos partidos conservadores porque no quieren cambiar las cosas partidos de izquierdas conservadores partidos de derechas conservadores porque no quieren tocar

eso a lo que tanto miedo parece que se tiene en este parlamento que es la ley de territorios históricos nosotros proponíamos lo que nosotros pensábamos que era el mejor medio para abordar esa reforma podría haber tres

amaitzen joan mesedez haber presentado nosotros una proposición de ley para reformar la

pretencioso que un solo parlamentario presentara una modificación de ese nivel lo que proponíamos es que el parlamento trajera su propuesta y entre todos entre todos los grupos pudiéramos modificarla y hacer

ustedes no quieren ustedes prefieren marear la perdiz ustedes prefieren posponer el debate y las soluciones y nosotros seguiremos insistiendo gracias

gracias presidenta efectivamente hemos llegado a un acuerdo de enmienda de transacción

nacionalista y eh bildu es una enmienda que entendemos satisface el planteamiento

del grupo socialista porque permite desarrollar con un trato lógico los efectivos que nos planteábamos en este parlamento con respecto a la revisión del entramado institucional se parte en la pasada legislatura de un informe del gobierno vasco sobre duplicidades se constituye una comisión de trabajo

y la presente legislatura si se aprueba esta

será heredera de esa comisión especial de la pasada legislatura que analizará

en euskadi y que planteará medidas concretas a desarrollar por parte de este parlamento y por parte del gobierno en su caso medidas legislativas

medidas de eliminación de duplicidades e ineficiencias y medidas también de coordinación interinstitucional que sin duda redunden

la mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos

que recogía nuestra enmienda a la totalidad y que también se recoge en la proposición no de ley del grupo socialista de creación de una ponencia para la revisión del entramado institucional

hoy ocurra es probablemente de que hay que tener sentido si es que esta ponencia

siendo aprobada por esta cámara hoy mismo pero lo decía en mi primera intervención esta ponencia no impide que trabajemos en paralelo en la tramitación y aprobación de la ley municipal llevamos treinta años de retraso

parlamentario hace veinte años en esta cámara entre el año noventa y uno y noventa y tres antes de ser alcalde

en el calendario legislativo de todos los gobiernos de euskadi y sin embargo estamos donde estamos

ordinario de aprobar la admisión a tramite de la proposición de ley municipal presentado por el grupo socialista

no necesariamente los trabajos tienen que ser excluyentes pueden ser concluyentes

perseguimos en definitiva es que tengamos capacidad de aprobar en este caso leyes pendientes como la municipal que es largamente esperada y deseada por el conjunto de los municipios

en este país y todos sabemos lo que tarda en aprobarse un proyecto de ley tarda

y tenemos una proposición de ley que es heredera del anterior proyecto de ley presentada la pasada legislatura que ha pasado los trámites de informes sectoriales informes de legalidad

de consultas etcétera aprovechemos ese capital que tenemos de la pasada legislatura pongamos en marcha

de ley tramitemos la ley de parlamento y garantizaremos que por fin

la ley municipal a propósito entiendo que el partido popular va a votar a favor de la admisión a trámite por la intervención del señor damborenea le agradezco desde aquí el apoyo

de su intervención aquí espero que se refleje esa lógica también en el próximo pleno con

y que en ese sentido seamos capaces entre todos de empezar de verdad a poder trabajar realmente en que

y en cuanto a la constitución de la ponencia decirle que nos parece también positivo y enriquecedor que la ponencia analice también

y la administración del gobierno de españa tratamos de poner en marcha las medidas necesarias para buscar esa eficacia y eficiencia y también en ese sentido es positivo que se realice el conjunto de actuación de todas las administraciones que aquí intervienen en euskadi y que

del estado en euskadi como decía el portavoz de eh bildu

y que de ahí saquemos las recomendaciones y las medidas necesarias para conseguir ecomo le decíac ese gran objetivo que tenemos entre todos

en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía muchas gracias

lehenengo interbentzioan y al señor maneiro usted que se ha permitido hoy

de que tenemos que traernos los puntos más preparados yo lo que le digo es que por favor

de una ley nos diga exactamente qué artículos de la ley quiere cambiar y cómo lo quiere hacer

porque hay artículos de esa ley que para poder cambiarlos afectan a una ley

por lo tanto deberíamos cambiar también el estatuto de autonomía en la mayoría de los puntos que afectan al desarrollo que es un ley de desarrollo que es la ley de territorios históricos porque usted no quiere usted utiliza la

porque si quiere acabar con duplicidades porque no hace mención a la gran duplicidad que existe en el tema de las policías eso no es un gasto irracional el tener una policía integral con todas las competencias

tener un ratio de siete policías por mil habitantes cuando en europa se marcan dos policías por mil habitantes

señor maneiro esto no es un tema de ser conservador de izquierdas o de derechas sino es un tema de hacer las cosas bien

de hecho como le he dicho antes usted parte de un razonamiento

y la existencia de una comisión que hizo su trabajo en cambio no dice que esa comisión escuchó muchas opiniones muchos expertos muy divergentes había de todo puede que haya duplicidades

usted pensará que unas son duplicidades y otras no nosotros pensamos igual de otra forma entonces

en volver a hacer una reflexión partiendo de una fotografía real

y a partir de ahí decidir o adoptar las medidas que sean necesarias como le he dicho anteriormente el informe del que parte es un informe que el

y en nuestra opinión adolecía de diversas carencias como puede ser que en ningún momento

y los ayuntamientos cuál era su opinión de hecho lo reconocen las propias auditoras que las elecciones

forales habían sido recientemente celebradas

sin acordar ninguna metodología de participación por parte de esas entidades por lo tanto el propio informe

tal y como lo reconoce la propia consultora además

reconoció en la comisión en su primera comparecencia que un informe

y que llegaban dónde llegaban de hecho entre los grupos no existía un acuerdo

muchos expertos también decían que no están de acuerdo con el concepto

no solo con el de duplicidad sino con el de ineficiencias el informe

además usted se basa en la existencia de ineficiencias tal y como

en su introducción dice que no incluye análisis en términos de eficacia o eficiencia en las actuaciones realizadas por las diferentes instituciones

y al final es cuando incluye un capítulo que incluso cuantifica las ineficiencias en

se les preguntó a las empresas responsables a qué se debe esto y eludieron dar ninguna respuesta además este informe lo tiene en cuenta la administración general del estado

hay una ausencia total de la aclaración de la administración general del estado en la comunidad autónoma

importantísimas como puede ser la de infraestructuras aeropuertos etcétera por lo tanto lo vuelvo a repetir no tenemos ningún inconveniente en llevar a cabo una nueva reflexión para partir de una foto real

yo le vuelvo a repetir modificando la lth no se consigue ninguno de esos objetivos que usted plantea no son las leyes las que crean las duplicidades

ni lo que estaba planteando de la fiscalidad ni lo que usted no le gusta de las competencias forales ni nada de eso modificando la lth no conseguimos absolutamente

pero evidentemente como todas las leyes puede ser mejorables y a lo mejor modificando algún reparto de competencias

alguno de los dos o los dos dejan de invadirse competencias sería digamos la mejor aportación que se podría hacer a esa modificación

circunstancia que a usted se le ha olvidado porque ahora ellos sí gobiernan una diputación foral y luego nos vienen aquí a decir que es que en eibar

pero claro como gobiernan una diputación foral aprueban lo que ellos quieren y como ellos quieren y evidentemente sin coordinarse con absolutamente nadie más

y desigualdades primero se producen y luego venimos aquí a denunciarlas lo cual ya empieza a ser curioso en el nuevo grupo que tenemos

al representante de bildu que tiene una obsesión con la guardia civil y las duplicidades le aseguro que la guardia civil entre sus prioridades ni secundarias ni terciarias ni últimas está la lth creo que no se lo han planteado nunca no les ha preocupado nunca

me dice que en base a lo que yo le he dicho votaremos a favor de la toma en consideración de su proposición de ley

usted nos dice que su proyecto su proposición de ley es continuista del proyecto de ley

porque lo sabe pero nosotros por respeto a este acuerdo que han conseguido ustedes hoy en esta cámara de crear una ponencia para estudiar eso evidentemente en coherencia con su propuesta en coherencia con su voto de hoy

porque siendo coherentes o debatimos estudiamos las enmiendas

que va a modificar las competencias institucionales por lo menos de ayuntamientos y diputaciones y susceptible de modificar la lth es contradictorio con la decisión de este parlamento hoy de crear una ponencia para estudiar eso

con su propuesta de hoy pues votaremos en contra de su iniciativa de mañana muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna eztabaida

resultado de la votación setenta y cinco votos emitidos sesenta y cuatro votos a favor once abstenciones beraz

legebiltzarburua legebiltzarkideok lehendakari eguerdion el grupo socialista

un anteproyecto de ley que está provocando indignación y también para instar al gobierno vasco a continuar la defensa de nuestras competencias en educación iniciada por el gobierno del lehendakari patxi lópez porque los socialistas vascos

este anteproyecto igual que lo hace el consejo escolar de euskadi agentes sociales sindicatos asociaciones de padres y madres de euskadi y nos parece perjudicial desde dos perspectivas una

y el aumento de los obstáculos al alumnado para su avance para su progreso académico y otra la intromisión en las competencias educativas recogidas en el estatuto de autonomía

que está demoliendo los pilares del estado de bienestar que hemos disfrutado hasta ahora beneficiando a los más pudientes

y abandonando a su suerte a los expulsados del sistema

esta reforma educativa es selectiva y segregadora lo que disminuirá las posibilidades de desarrollo personal y de promoción social que la educación ofrecía hasta ahora a todos los jóvenes y expulsará del sistema precisamente a quienes más lo necesitan para acceder a la igualdad de oportunidad por eso es también una ley injusta

nuestros niños y nuestros jóvenes nuestras niñas y nuestras jóvenes su futuro y sin embargo el debate

posición prepotente sin diálogo el gobierno del señor rajoy anuncia una ley más alentada por la ideología que por la calidad de la educación

una ley basada en una concepción rancia y elitista de la educación que en algunos aspectos nos devuelve cuarenta años atrás sin embargo en euskadi

ha parado el golpe manteniendo la calidad y la oferta del sistema educativo vasco

en nuestras competencias educativas mediante el inicio de un recurso ante el tribunal constitucional aún así tenemos que entender

necesitamos trabajar por mantener la igualdad de oportunidades y los niveles conseguidos

pretendiendo cambiar el modelo que tenemos de oportunidades para todos por otro clasista que dejará en la cuneta a los que más necesitan el apoyo público y esos

son también los niños y niñas de nuestra amplia clase media que si tienen alguna dificultad de aprendizaje subsanable con una atención más directa verán reducidos los apoyos para esa atención y abocados a centros educativos de segundo nivel en el ranking que pretenden hacer en lo que respecta al autogobierno

de la educación porque traslada al gobierno central decisiones que corresponden a nuestras competencias en educación y todo este afán uniformizador por una obsesión centralista sin base en criterios educativos

a algunos aspectos principales de esta contra reforma empezando por los aspectos que más perjudican directamente al estudiante

habla de la necesidad de reducir las tasas de fracaso y el abandono escolar pero actúa en sentido contrario poniendo reválidas corregidas por profesores que no son del centro y desviando a gran parte del alumnado a una fp básica devaluada

de mayor nivel cómo va a disminuir entonces el abandono escolar

todas las pasarelas decididas en la loe y en la ley de economía sostenible para pasar

a otro e incluso de la fp a bachillerato a más obstáculos de verdad creen que menos abandono están introduciendo medidas durísimas segregadoras sin ningún aval científico porque la carrera de obstáculos que quieren aplicar no se hace

en presupuestos progresistas pueden lograrse unos resultados educativos muy buenos y equitativos fíjense ustedes

no supere el diez por ciento un objetivo realmente ambicioso

el noventa y uno coma uno por ciento de los matriculados eso sin olvidar que tenemos un sistema muy equitativo coherente

que lo que dicen es que los sistemas educativos de más elevado rendimiento

los más equitativos es decir aquellos en los que los estatus socio económicos provocan menores diferencias en los resultados de los alumnos así que el señor rajoy

mención especial merece la depreciación de la formación profesional que producirá esta ley se vuelve a una concepción abandonada hace mucho tiempo de considerar a la formación profesional

los múltiples filtros que se le ponen otra vez todo esto en euskadi es aún mayor desastre porque tenemos una fp excelente que es modelo para otras comunidades y con lo que se propone no tendremos más calidad sino

con escasa cualificación académica que saldrá demasiado pronto al mercado de trabajo y no es eso precisamente lo que necesita nuestro sistema productivo sino todo lo contrario

el aspecto más conservador aparece por ejemplo en la eliminación de educación para la ciudadanía

y en la introducción también de una alternativa evaluable a la religión además de aumentar

también elimina el papel de la escuela pública como motor del sistema

al introducir la demanda social como un elemento principal en la matriculación del alumnado lo que abre la puerta a un crecimiento desmedido de algunos centros concertados

refleja también una verdadera obsesión por la segregación promueve centros diferenciados por especialización curricular lo que implica separar los alumnos en centros distintos por su rendimiento académico centros que podrán además tener más financiación y seleccionar a su alumnado todo esto lleva irremediablemente a un sistema formado por centros de primera que concentran al alumnado de mayor rendimiento y otro de segunda la ley también segrega por sexo

fíjense que en este caso no se trata de prohibir esa segregación

quien quiera colegios de ese tipo que se lo pague y ya está

que empleen el dinero público en el sentido de fomentar la igualdad en euskadi además de lo comentado esta ley nos provoca aún más problemas específicos para empezar el gobierno del señor rajoy está usando la crisis

hasta el punto de imponer medidas simplemente organizativas como el ratio de profesor alumno o el número de horas por profesor

es una ofensa gratuita que indica la nula sensibilidad del partido popular hacia cualquier diferencia y lo que se aleja definitivamente del autogobierno

es que el ministerio decidirá de hecho el cien por ciento de las asignaturas troncales de su currículum se entiende termino haciendo un llamamiento a la consejera de educación señora consejera y al lehendakari

con firmeza cuando inició un recurso ante el tribunal constitucional pero siento tener que decir que la actuación de la nueva consejera después de recibir un desplante del ministro wert

qué declaración es señora consejera que ha recibido un chasco al oír la negativa

no sabía las dificultades que se iba a encontrar no lo había preparado de todas formas lo que importa ahora es qué piensa hacer y en ese sentido las líneas rojas que ha declarado para definir la postura del actual gobierno no son muy alentadoras

y a nuestras competencias en ambas cosas estamos de acuerdo pero no son líneas rojas también la formación profesional la creación de centros especializados

entre otras barbaridades si queremos solucionar el problema deberíamos afrontar lo que nos perjudica no solucionar solo lo que parece que nos diferencia en cualquier caso el anuncio del señor erkoreka de que el señor erkoreka defenderá con uñas y dientes nuestras competencias lo siento pero parece pura retórica después de que la consejera haya anunciado que el gobierno vasco descarta la vía judicial

a las iniciativas en el congreso controlado por la mayoría absoluta del partido popular por eso agradezco la transacción alcanzada con el pnv para sumar fuerzas contra esta contrarreforma e invito al resto de grupos en cuanto a la propuesta de bildu

lo que ese grupo nos ha señalado como sus límites irrenunciables uno el compromiso de negarse a aplicar la ley en caso de que se aprobara nosotros los socialistas somos un partido que hace propuestas busca alianzas

recurre a los tribunales se manifiesta pero no desobedece las leyes la segunda propuesta irrenunciable de bildu es la necesidad de establecer espacios de colaboración con la generalitat de cataluña para este asunto de la lomce

por qué no propone establecer relaciones con todas las comunidades autónomas puesto que se suman fuerzas y a todas afectan los problemas que acabo de describir por lo tanto les invito a todos a sumarse a la transacción del grupo nacionalistas vascos y el grupo socialista

erasorik larri eta handiena da el borrador de la ley de mejora

del gobierno es el mayor ataque y la mayor agresión contra el euskera y el sistema educativo vasco

plantea la necesidad de que este anteproyecto de lomce

ikusi besterik ez dago euskal herriko sindikatu gehienak esaten dutena nos oponemos a este anteproyecto de reforma educativo por considerarlo impositor centralizador uniformador españolizante regresivo

segregador y elitista eta ikusi besterik ez dago herritarrek sare sozialetan esaten ari direna esta reforma es un retroceso y no podemos volver atrás quieren acabar con todo aquello que sea distinto al castellano no podemos permitir este acoso y derribo al euskera

la recentralización del estado y limitar nuestra capacidad para decidir en euskal herria nuestra propia educación un ataque en toda regla al euskera

y pone el camino a su desaparición abre el camino para el adoctrinamiento ideológico político y religioso la españolización

busca el control de toda la educación imponiendo exámenes generales obligatorios y evaluaciones externas

y haciendo desconfiar a los ciudadanos y a las ciudadanas de la labor de los centros y de sus profesionales no quiere la participación de los diferentes agentes educativos en la vida de los centros ni la gestión democrática de estos busca la mercantilización

busca la privatización de los servicios públicos en definitiva busca borrar más de treinta años de escuela democrática vasca para llevarnos a otros tiempos la gravedad del momento por lo tanto es máxima

además el parlamento vasco insta al gobierno vasco a continuar los trabajos iniciados en la anterior legislatura y usted lo decía siguiendo el trabajo realizado

pero si ya sabemos cuál ha sido el producto final no tiene más que ver la extra de los funcionarios

por lo tanto no podemos ser ingenuos y tenemos que saber perfectamente que si es que aplicamos aquí la lomce es decir si no le hacemos planto si no hacemos frente

por lo tanto me parece un cierto grado de ingenuidad por su parte cuando ha firmado con el partido nacionalista vasco seguir continuando defendiendo a las competencias ya lo hemos visto no se lo vuelvo a repetir eta bukatze aldera baita ere

hitz egin akordatu adostu eta madrilari aurre egin es al gobierno vasco al que le toca actuar con la máxima contundencia en la defensa de un patrimonio pedagógico que nos corresponde

zer esanik ez lanbide heziketak duen ospe eta garrantziaz por tanto no aceptamos ningún cambio cuya necesidad no esté avalada con datos de resultados de cada uno de los sistemas educativos a los que va a afectar nuestro sistema educativo corre un claro riesgo de empeoramiento ya que

establece como objetivos para el estado baina zein da erreforma honen helburuaa

en lo que respeta a nuestro ámbito político administrativo el anteproyecto de ley debiera prestar especial cuidado a la consecución del objetivo que es el conocimiento y uso de ambas lenguas tanto del euskera como del castellano en cambio se empeña en regular la proporción

el objetivo nosotros entendemos que cada administración educativa debe determinar la lengua o las lenguas vehiculares

del territorio ha quedado claro que el pp no asume como lenguas de estado las lenguas que no sean el castellano para ustedes las lenguas oficiales diferentes al castellano

el texto solamente repara en la imposibilidad de excluir al castellano y se olvida de citar la imposibilidad de excluir la lengua cooficial de todos modos el sistema educativo vasco de ipso se imparte en castellano incluso en el modelo quinientos

después de la experiencia adquirida en las dos últimas décadas y tras las investigaciones realizadas

sobre todo en los núcleos de mayor población en cambio el mismo alumnado

y sino los obtuviera no se preocupe porque tomaríamos las oportunas medidas para que eso fuese así arazorik ez zegoen tokian

finkatuko ez duena no como se hace en el anteproyecto en el que el euskera está por debajo del castellano

no de mera coexistencia por tanto el pp haría una contribución enorme si la lengua y literatura cooficiales pasasen del bloque de especificas a troncales eskumen banaketari dagokionez

sí gracias presidenta me parece bastante

de la justificación de la proposición no de ley planteada por el grupo socialistas vascos que decía así tal y como hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación

con lo cual quedaba claro para entonces el cuatro de diciembre si no recuerdo mal que fue cuando se registró la iniciativa es que era borrador lo que teníamos encima de la mesa y por lo tanto lo que cabía hacer en esa situación era informarse bien del anteproyecto que podía ser definitivo y a partir de ahí plantear un debate serio y riguroso sobre la materia que es creo yo lo que no se ha hecho ni durante el día de hoy ni

de los grupos políticos yo creo que es un asunto lo suficientemente

seriamente y no es debatir seriamente debatir sobre un borrador y no es debatir seriamente debatir con brocha gorda

como es la educación nosotros en el congreso de los diputados plantearemos nuestras reivindicaciones nuestras propuestas y nuestras enmiendas teniendo en cuenta que los ciudadanos necesitan la mejor ley educativa posible una ley que dure al menos veinte años una ley que se centre de verdad en reformar de verdad el modelo educativo y la educación en españa que falta le hace y

no es españolizar a nadie porque no hay que españolizar a nadie sino en sobretodo construir ciudadanos libres

y críticos yo creo que es el tipo de ley que necesitamos una ley construida con el máximo consenso posible sin sectarismos una ley que no sea la ley de un ministro en concreto ni de una gobierno específico sino una ley como digo

muchos años nosotros efectivamente rechazamos algunas de las medidas que este borrador este anteproyecto recoge y además respetamos también que el resto de grupos haga críticas a este anteproyecto y que haga críticas argumentadas muchas de ellas estarán justificadas otras en nuestra opinión nosotros sí que rechazamos algunas de las medidas la supresión de educación para la ciudadanía efectivamente las concesiones que parece que ha habido a la iglesia católica las concesiones a la escuela concertada la segregación por sexos

es decir sí vemos que hay cosas que no nos gustan y sí queremos en cambio que se garantice

los socialistas guipuzcoanos la semana pasada calificaron como rancio nacionalismo español y que es algo tan sencillo de entender como que los alumnos puedan si quieren estudiar en español en cualquier parte de españa esto nos parece algo absolutamente

central sigue sin garantizar no ha garantizado todavía

chaval pueda estudiar en castellano en cualquier parte de españa en determinadas comunidades autónomas no se puede hacer lo mismo que defendemos que se pueda estudiar en euskera en euskadi por supuesto pensamos que también

en castellano en español en cualquier parte de españa también en cataluña también en euskadi nosotros esperamos que al final del proceso tengamos una ley mejor que la actual

del país una ley que supere el disparate de que tengamos diecisiete modelos educativos en españa una ley que ni siquiera tenga que hablar de derechos lingüísticos porque dichos derechos lingüísticos estarán perfectamente respetados en cualquier lugar de españa una ley

igualitaria de aplicación en cualquier parte del país que sirva para construir ciudadanos bien formados críticos

moderna una ley consensuada una ley pensada no en las próximas elecciones no en los próximos dos cuatro años sino en los próximos veinte años

a la educación hay una serie de objetivos que debería tener esta ley que finalmente se apruebe disminuir la tasa de abandono educativo temprano

mejorar el nivel de conocimientos en materias prioritarias incrementar la autonomía de los centros docentes mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras entre otros una ley que iguale contenidos curriculares y modelos educativos que unifique los contenidos que estudien todos los escolares españoles y desde luego una ley que mejore la educación en el conjunto de españa y también

lo primordial y muchos de los temas que se han sacado durante las últimas semanas son realmente pájaros y flores y no van a lo importante lo importante es poder tener la mejor ley educativa posible y reformar el modelo educativo en el conjunto del país hace dicho esto claro llama la atención las críticas de los nacionalistas a la pretensión de tratar de garantizar que se pueda estudiar en español

hablar de la lengua como nervio principal de nuestra condición de nación o a distintos sindicatos nacionalistas decir que este borrador supone un ataque directo al euskera

derecho y eje de nuestro sistema educativo y solamente por defender la libertad de elección lingüística

en euskadi en cataluña y en cualquier parte de españa argumentos por lo tanto que demuestran que los nacionalistas no quieren una buena educación quieren una educación al servicio de sus intereses políticos al servicio de sus ensoñaciones

de los ciudadanos y al servicio de la construcción nacional y evidentemente esto hay que cambiarlo es curioso escuchar al representante de eh bildu hablando de adoctrinamiento ideológico y de imposición cuando está

durante años y quieren seguir intentando hacer

nos negamos en conclusión no vamos a pedir la retirada del borrador del proyecto lo que vamos a hacer es tratar de mejorar este proyecto con las correspondientes enmiendas y argumentos que presentaremos en el congreso de los diputados ya digo podemos

incluso algunas nosotros las compartimos pero ciertamente lo que está recogido en las enmiendas que luego se van a votar no creo que vayan a la raíz de los problemas no creo que vayan a lo importante

aspectos competenciales y lingüísticos pero para nada hablan de la calidad de la educación que es algo en lo que todos deberíamos centrarnos nada más y gracias

sinceramente me gustaría poder rebatir las críticas

razonables la verdad apenas he escuchado nada razonable de los discursos

no ya los borradores ni el cuarto ni el tercero ni el último

de lo que significa esta ley porque son todo soflamas soflamas de lo más barato elitismo recentralización

nos quitan las competencias vienen a traer

sin ninguna base porque esta es una ley que viene a defender una educación que forme a las personas una educación que piensa en las personas una educación integral al servicio de las personas una

que eduque en valores y que trate de formar ciudadanos libres iguales ciudadanos críticos y desde luego que tiene una serie de objetivos que no son los que se han puesto de manifiesto aquí que tiene como objetivo defender desde luego defender la calidad defender la equidad y defender la equidad significa pensar en el conjunto de la ciudadanía española esta es una ley para el conjunto de españa no pensemos que si aquí en no sé qué indicadores estamos mejor que en andalucía o mejor que en castilla la mancha no no es que esta es una ley

al conjunto del sistema educativo en españa un sistema educativo que tiene deficiencias y que tenemos que pensar en como mejorar esas deficiencias un sistema educativo que viene

porque estamos en un modelo diseñado por el partido socialista

y es verdad que hay cosas que han funcionado pero hay muchas otras que no y que es necesario tras tantos años hacer una valoración fijarnos en lo que está pasando en los países de nuestro entorno

y poder poner encima de la mesa elementos de corrección en aquellos aspectos

pretende poner encima de la mesa esas correcciones en aquello que no funciona pero pretende hablar también de la educación para el empleo en un momento que eso preocupa

y pretende hablar de cómo potenciamos la formación profesional no de cómo la devaluamos señor reyes de cómo potenciamos y reforzamos la formación profesional y pretende mejorar el nivel de conocimientos y sobre todo también establecer unos sistemas de evaluación que permitan

el cumplimiento de los objetivos claro que sí porque hasta ahora no ha habido ningún tipo de evaluación

las únicas referencias que tenemos son los informes pisa ahora me voy a referir a ellos

son informes internacionales porque en este país no ha habido ningún sistema de evaluación en estos años y por supuesto que esta es una ley que pretende defender la libertad y desde luego no solo respeta

sino que viene a incrementar la autonomía de los centros pero sobre todo lo que quiere es reforzar el papel del profesorado y plantea la puesta en marcha

tenemos que reforzar y dignificar la figura docente el papel de los profesores no hay sistema educativo que aguante que pueda mirar el futuro

motivados y necesitamos que vayan que sean los mejores los que vayan a la docencia no como lo que está pasando hoy que

que los mejores en nuestro país se dediquen a la docencia necesitamos reforzar su papel y para eso hay elementos que refuerzan su papel el papel

y de la autonomía de los centros y de la función directiva y también los retos que tenemos por delante el inglés por supuesto que esta es una ley para mejorar

y defender la igualdad de oportunidades que es de lo que se trata fundamentalmente defender la igualdad de oportunidades esta es una ley que trata de acometer una situación y es la situación de que la educación en españa no es buena

en españa son del veintisiete por ciento cuando en la unión europea apenas llegan al trece coma seis y aquí estamos en el veintisiete en el doble

el abandono casi del treinta por ciento la media de la unión europea

ya no es el momento de hablar de recursos el discurso del dinero por alumno o los alumnos por profesor

que no funcionan ya porque este país ya ha hecho mucho esfuerzo

los datos han cambiado y ahora tenemos una situación en la que resulta que en españa se gastan casi diez mil doscientos dólares por alumno

y que nuestra ratio de profesores alumno es en españa de diez alumnos por profesor en cambio la media de la ocde es de catorce alumnos por profesor los datos del dos mil doce los datos internacionales que nos dicen

de recursos sino de cómo se gastan y de cómo se emplean los recursos en la educación en españa tenemos una educación que no está mejorando que los índices además van a peor y además si nos fijamos en el país vasco señor reyes señores nacionalistas no podemos decir oiga es que

no es que la educación en euskadi también ha perdido peldaños es que según el del dos mil nueve en comprensión lectora que es algo que es básico en los elementos troncales a la hora de medir de capacitación en la educación comprensión lectora euskadi ha quedado la séptima en el índice de comunidades autónomas y nos supera madrid y nos supera castilla y león y nos supera cataluña y la rioja y navarra y aragón nos superan comunidades autónomas que gastan bastante menos que nosotros

tendremos cosas que mejorar aquí también que no solo nos tenemos que comparar en los indicadores que nos interesan tenemos que pensar que los informes internacionales dicen que hay comunidades autónomas españolas que estaban muy por debajo de euskadi hace unos años y que ahora ya nos superan en casi todos los indicadores de los informes pisa

que es muy importante ponerlo de manifiesto el sistema ha demostrado que no es capaz de dar respuesta a buena parte de los problemas a los que se enfrenta hablar de equidad arquitectura del sistema educativo significa hablar de igualdad de oportunidades señor reyes y esta no es una ley segregada para nada

porque los alumnos tengan que decir tengan que decidir puedan decidir puedan optar cuál es su camino el camino que mejor se adapta a sus posibilidades y a sus capacidades

la edad en la que tiene lugar la primera elección eso que ustedes llaman segregación

en alemania a los once años en italia a los catorce

a los catorce en los países bajos a los doce aquí a los dieciséis

dos cursos la posibilidad de que los alumnos elijan sus itinerarios eso es segregar no eso es dar capacidad a los alumnos para decidir cuál es en función de sus

poder elegir cuál es su camino mire en este país un treinta por ciento se queda fuera de juego se queda fuera del sistema ni siquiera alcanza el título de la eso

los abocan al fracaso a la imposibilidad de encontrar un empleo sin ningún título

de los que continúan en el camino otro tercio se queda fuera sin alcanzar

dos tercios optan por el bachillerato solo un tercio por la formación profesional no voy a hablar luego de

en alemania es justo al revés dos tercios a la formación profesional un tercio hacia el bachillerato aquí estamos al revés al revés que los socios europeos

que mejores índices están proporcionando en todos los indicadores y también en el empleo juvenil tenemos que potenciar

porque todos los alumnos tienen talento pero desde luego

ese talento no es el mismo no es de la misma naturaleza en todas las personas

las herramientas suficientes para que cada alumno pueda elegir cuál es su mejor camino este

que cada uno pueda aspirar a desarrollar su vida

es un sistema que tiene que permitir y que tiene que poner al alcance de todos

eskerrik asko señor oyarzabal voy a empezar por tratar de darle respuesta a usted

en el fragor de los datos que como hacen en madrid están

utilizados a medias es verdad y yo le emplazo a que convoque una ponencia para analizar simplemente los datos simplemente a que se lea los informes del consejo escolar de euskadi

aprobados por unanimidad por todos los agentes kristau eskola incluido

de la comunidad educativa de euskadi que no dice lo que ustedes sino todo lo contrario todos los agentes del consejo escolar de euskadi del consejo vasco de la formación profesional dicen lo contrario que usted dice argumentando con datos

y dicen eso no le gustará pero lo dice y es la comunidad educativa

mire yo cuando hablo estos días de este tema no hablo diciendo es que hay que subir

y soy socialista demasiados años preocupado por la igualdad por el ascensor social para todos para que esto no me preocupe profundamente

no hablo de detalles que una ley se podría hacer para mejorar cosas concretas digo que estoy verdaderamente asustado

volviera a vivir un sistema educativo que nadie pronunció por cierto a la era franquista no se haga la víctima

pero un sistema educativo como el que yo viví que tiene

muchos parecidos con esto yo a los diez años hice un examen de ingreso a los catorce hice una revalida elemental

la del bachiller superior el último año del preu bien fueron controles

porque unos pocos lo pasamos pero la mayor parte de la población se formó en un sistema de mala calidad con malos medios educativos y constituyó

en una época además al inicio de la democracia en la que

a los dieciséis años en españa no se escolarizaba todavía todo el mundo

a leyes hechas por los socialistas que aquí en euskadi tiene un gran consenso que da un sustrato de tranquilidad y fortaleza al sistema educativo y ha permitido unos resultados extraordinarios

habrá que cambiar otras cosas castilla la mancha no la gobernamos nosotros no tiene malos resultados no es que haya que hacer algo uniforme para avanzar lo que hay que hacer es atender a cada uno según sus necesidades y no perder de vista los objetivos

voy a hablar solo de la formación profesional es falso mentiroso decir que alguien que haya leído este texto puede interpretar que se quiere mejorar la formación profesional mire la formación profesional que existe ahora aparte de tener prestigio mno solo aquí también en andalucíac permite

y la ley de economía sostenible que ustedes no quieren aplicar cerraba el ciclo para que por el sistema transiten las personas que se están formando para avanzar de un ciclo formativo básico a un ciclo formativo de grado medio superior bachillerato sin trabas más

avanzar eso es lo que permite la ley lo que está escrito

para mejorarlos y para ver la fuerza que tiene el gobierno solo faltaría que además era ya el segundo y es el definitivo

es que el que no supere la reválida la de

o antes incluso si creen que su rendimiento es malo se va a la formación profesional básica de la cual no puede salir si no aprueba un examen que es otra especie de reválida y no hay otro camino no hay otra valoración

en formaciones de baja calidad que hacen otra vez mano de obra barata cuando aparte de ser injustos socialmente en esta comunidad lo que necesitamos es todo lo contrario esa es

que defiende este texto y léalo sino por favor bueno como nos dirigimos a gente

se ha enterado o lo lee lo puede ver si no luego tomando un café se lo leo

en el sistema dieciocho años y que no se puede pasar y que

indican que cuanto más se repite menos éxito y menos equitativo el sistema que eso no es la solución pero qué dice

porque los exámenes que tienen los que lo tienen de ámbito nacional

certificados que permiten el progreso pero diversifican según opciones personales y competencias

su partido imponer en españa no existe en ningún sitio y es algo que no puede superar

para acabar bueno bien su retórica habitual en fin reconoce que

perdón perdón pero vamos a ver yo le repito simplemente como mensaje que el gobierno no puede negarse a aplicar

y no puede negarse porque formamos parte de un sistema democrático y el fundamento de un sistema democrático es el cumplimiento de las leyes entre otros

es algo es algo que todos los grupos que pertenecen a un lugar donde se elaboran leyes deberían de tener claro oposición toda

no cumplir las leyes es otra cosa es negar el propio sistema

que está muy bien reclamar que los agentes participen pero los agentes fueron reclamados por el gobierno anterior por la señora celáa

acabo muchas gracias está hecho el informe del consejo escolar de euskadi

y todo eso está en marcha pero está bien sumarse a ello pero que nadie para solucionar

las actuaciones que ya socialmente junto con los partidos políticos se están dando

usted ha venido aquí con la misma postura del señor wert no quiere hablar con nadie no quiere acordar con nadie

falta de rigor en datos y es usted un irrespetuoso y voy a empezar porque sabe usted que los alumnos y las alumnas que están entrando

en magisterio las notas que se les está pidiendo y las notas medias que tienen lo sabe

entérese porque no es como ha dicho usted porque están pidiendo notas altas por lo tanto

primero aplíquese el rigor así mismo segunda cuestión

el artículo seis léase el artículo seis cuando define el tema del currículum

de las competencias de la administración que prácticamente se quedan en nada es decir el gobierno de aquí el gobierno actual

cómo que no el cincuenta por ciento del currículum lo definen las asignaturas troncales las matemáticas las ciencias la ciencia natural y social castellano

primera lengua extranjera eso lo define el currículum el cincuenta por ciento

y los valores y vamos a la tercera división que son las asignaturas de especialidad

sabe usted qué está aquí aquí está hizkuntza koofiziala es decir la cooficial el euskera el catalán está

educación artística y está la segunda lengua extranjera es decir

del castellano con respecto a las lenguas oficiales no existe pero le voy a poner otro ejemplo es decir vamos a hablar un poco de lo que usted decía usted decía no no no hay recentralización es prácticamente el cien por ciento

más las evaluaciones que las fija de todas las áreas el ministerio más las asignaturas troncales que lo mínimo y las asignaturas de especialidad y en las específicas lo mínimo lo fija el ministerio no

vamos a la parte del euskera eso sí la obligatoriedad del castellano la define clarísimamente disposición adicional treinta y nueve punto uno ahora del euskera sabe que dice bueno

del tema del euskera el tema de las lenguas de cada una de las comunidades se podrán distribuir en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos es decir se aprenden bien pero

en castellano que aprendan por lo tanto no me diga señor oyarzabal que no nos hemos leído y vamos a hacer un poco rigurosos lo que pasa es que tenía usted una papeleta muy difícil hoy aquí y nos ha venido con los datos de alemania de holanda y no sé de qué sitios sabe usted cuál es el fracaso escolar del sistema educativo vasco

el fracaso escolar ronda en el doce coma cinco sabe cuál es el objetivo de la unión europea llegar al diez por ciento en el año dos mil veinte se lo ha dicho el señor reyes es decir no venga diciendo que aquí de qué base han partido si no han analizado nada no han hablado con nadie no han escuchado a nadie y no quieren acordar con nadie por lo tanto

que es un anteproyecto de ley totalmente es oso larria y totalmente inaceptable

sí o sí va a aprobar esta ley sí o sí

que tenemos que ser conscientes de eso zuk esan diozu hombre si cambiaran esto con el tema del euskera

y la van a traer a nuestras aulas beraz nik uste dut

señor reyes lo tenemos muy claro que no queremos que se aplique porque usted me dice

pero es que está clarísimo señor reyes que el no negarse a aplicar la ley es aplicarla y aquí se va a aplicar se lo he dicho anteriormente mire usted lo que ha pasado con lo que era la paga extra

a no poder pagar la paga extra de los funcionarios el aplicar la ley básica del estado simple y llanamente y eso es lo mismo que va a pasar aquí beraz

ahalegin guztiak quiero pensar que ustedes hubiesen actuado de la misma manera con responsabilidad si hubiesen seguido en el gobierno pero bueno nos quedará esa duda

porque reproduce fielmente las respuestas que él da en el congreso cuando no sabe por dónde salir este texto es un intento de homogeneización de los sistemas educativos y

ustedes vienen con lo que realmente les gusta que es con el café para todos y nosotros no estamos dispuestos a ello

ya se lo he dicho antes lo que le pedimos al ministro es un análisis riguroso

de los datos que hacen que sea necesario o que sea idóneo hacer una reforma como la que se nos está planteando existe o no existe un estudio se lo he preguntado antes y no me lo ha dicho para que avalen estos cambios

en qué se basa nos pretenden imponer medidas para solucionar problemas que nosotros a día de hoy no tenemos

créame lo hemos intentado pero no nos han dejado ustedes otros remedio que estar en contra qué ha hecho el pp vasco para defender nuestras competencias del estatuto

el sistema educativo vasco nada hasta ahora nada si le importase lo más mínimo el sistema educativo vasco hubiesen tratado de modificar este anteproyecto de ley pero como el señor basagoiti hace meses ya calificó la reforma como perfecta ninguno de ustedes ni siquiera los que conocen perfectamente el alcance del estatuto

un vaciado de la competencia autonómica para desarrollar el currículo la necesidad de guardar una coherencia entre los diferentes sistemas no justifica en absoluto el grado de informidad que ustedes proponen por tanto

del artículo dieciséis del estatuto y también les exigimos respeto a la legislación lingüística la comunidad autónoma de euskadi tiene dos lenguas oficiales

al mismo nivel que la lengua y la literatura castellana el sistema educativo vasco se basa en dos principios consensuados en este mismo parlamento por un lado

pero por otro lado hay otro principio que es al que a usted siempre se le olvida que es la obligación del alumnado

práctico suficiente en las dos lenguas oficiales tanto en euskera como en castellano ustedes están siendo cómplices de la ruptura de estos dos principios acordados en este parlamento

y de evitar que nuestro sistema educativo sufra un retroceso no sé ustedes pero eaj pnv va a seguir peleando en la defensa del modelo educativo vasco eskerrik asko

varios borradores de esta ley y creo que esta es una buena ley y desde luego se basa en muchos informes porque nosotros le recuerdo que

presentamos una ley de la calidad en el último tramo de la legislatura del gobierno

tumbó inmediatamente pero es verdad que llevábamos trabajando siete años y en el octavo año de gobierno pusimos en marcha una ley que ustedes tumbaron al mes siguiente de llegar al gobierno

sobre la base de esos aspectos y la experiencia de los últimos ocho años y los indicadores de los últimos ocho años se ha planteado esta nueva ley en materia lingüística cuáles son las competencias que se invaden

la constitución qué reclama como competencia propia del estado en materia educativas entre otras cosas la homologación de títulos las pruebas nacionales

sus traumas de otros tiempos porque lo que usted llama reválidas que se está planteando como prueba de bachillerato hay dos pruebas que van a ser pruebas de nivel la prueba final de la eso y la prueba final de bachillerato que hoy hay una ya

la prueba de acceso a la universidad que en vez de la selectividad va a ser una prueba final de bachillerato va a ser una prueba nacional cuál es la invasión de incompetencias

por la constitución y en materia lingüística lo único que recoge esta ley son simplemente

sobre todo para que se cumpla la ley en aquellos sitios donde no se está cumpliendo la ley en materia lingüística

de terminología que se especifica a unas asignaturas se les llama troncales y a otras específicas

porque el gobierno ha decidido y además respetuoso con las competencias que

el gobierno se reserva el diseño de los contenidos al menos en un cincuenta por ciento las materias troncales y para evitar que sea el gobierno central quien tenga que decidir contenidos

ha decidido separarlo para que sea competencia plena de las comunidades autónomas eso es entrometerse permitir que el catalán

el diseño curricular del catalán o del euskera aquí o el gallego sea competencia plena de la comunidad autónoma por eso porque la ley dice que las materias troncales que define cuáles son en un cincuenta por ciento será definido

por el gobierno central exactamente para ser respetuoso con las lenguas cooficiales

eso no es ningún tipo de intromisión simplemente esta ley pretende que se respete

pretende que se respete la presencia del español esté garantizada en cualquier lugar de españa como es natural

seguramente si hay algún problema de legalidad alguno de encargará de recurrirla pero esta es una ley que está perfectamente estudiada

con su apoyo sabíamos perfectamente cuál era su posición tanto del partido socialista como la de los partidos nacionalistas pero esta es una ley que tiene que garantizar la libertad y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos de españa hayan nacido donde hayan nacido tienen que garantizar la equidad no podemos pensar aquí con nosotros no va esto porque aquí no tenemos el mismo fracaso escolar que en andalucía que están en el cuarenta por ciento

pero que hay leyes que tienen que garantizar efectivamente que haya coherencia en nuestra sistema educativo porque eso es hablar de equidad y eso es hablar de libertad

y de oportunidades de las personas garantizar un marco de referencia para todos

con las competencias de las comunidades autónomas que en materia lingüística desde luego a euskadi

se reconoce y se establece que haya una presencia razonable

el decir que haya una presencia razonable que ni siquiera se especifica a qué se llama razonable y que eso tiene que ser decidido por la comunidad autónoma una presencia razonable del castellano

el gobierno de españa actuase como han actuado los gobiernos nacionalistas durante estos treinta años desde luego

porque sí ustedes tratan de uniformizar y ustedes tratan especialmente ustedes que han tenido responsabilidades señor agirrezabala en el sistema educativo durante muchísimos años sí porque ustedes que parece que aquí no han tenido nada que ver ustedes han tenido responsabilidades casi durante quince años al frente de la educación de este país han cumplido las leyes

en muchos casos de aquella manera bordeando la legalidad vulnerando derechos en muchas ocasiones nosotros tratamos

el derecho de las personas también a educarse sin manipulaciones despolitizar la educación y que nuestro sistema educativo

diecisiete sistemas educativos contradictorios y opuestos necesitamos un sistema educativo en españa que al menos sea coherente respetando las competencias de las comunidades autónomas pero que sea que ayude a nuestro país a progresar esta es una ley

del pasado eso sí que es rancio y eso sí que es obsoleto fijarnos en los países donde está funcionando mejor la educación eso es lo que hace esta ley si esta ley está trayendo aquí

me habla usted que le recuerda a otros tiempos aquí se están poniendo en marcha

y simplemente lo que pretenden es pertrechar de mejores herramientas a nuestros alumnos para enfrentarse a su vida especialmente a su vida

votación setenta y cinco votos emitidos cuarenta y tres votos a